y señores parlamentarios buenos días señor lehendakari miembros del gobierno mi intervención será breve es la presentación de la moción consecuencia de interpelación

ya se explicó de alguna manera en lo que fue la interpelación que este parlamentario mantuvo con la consejera de educación y cultura

ya recordamos en la interpelación que a lo largo de la novena legislatura se tramitaron o se debatieron distintas iniciativas en relación con la situación del cierre

excepcional museo chillida leku se sustanciaron en la pasada legislatura interesantes comparecencias en el pleno y en la comisión

ahí están referencias importantes en lo que son las declaraciones parlamentarias en relación con el excepcional museo vasco

entendemos que en esas comparecencias se aprobaron diferentes textos

de tres de febrero del dos mil once dijo que el parlamento vasco instaba al gobierno vasco a que junto con la diputación foral de gipuzkoa eventualmente si se acuerda con otras administraciones públicas implicadas se acuerde

sostenible y participado por las instituciones públicas que permita la reapertura del museo mediante una fórmula que garantice su viabilidad económica y de gestión así como el mantenimiento del espíritu que guió al artista en la creación de este espacio museístico y además

en aquel entonces y es bueno recordarlo hoy también en el contexto de esta iniciativa al gobierno vasco a que si como resultado del acuerdo las instituciones públicas

de museos de euskadi eso se decía en aquel entonces también en la comisión de cultura y juventud

se aprobó el siguiente texto el parlamento vasco insta al departamento de cultura del gobierno vasco y de la diputación foral de gipuzkoa a retomar cuanto antes

para lograr la más pronta reapertura del museo chillida leku mediante una fórmula de futuro que garantice su viabilidad económica y de gestión

nuevamente a que las instituciones implicadas en la negociación a respetar es una cuestión importante el carácter monográfico del espacio del museo

en el legado de eduardo chillida de modo que pueda seguir transmitiendo con coherencia y dignidad el proyecto original que el artista concibió y puso en marcha bueno son declaraciones han sido declaraciones de este

estamos hablando de lo mismo en una coherencia yo creo que argumental de necesidades en relación con esta cuestión que nos ocupa

una posición de este parlamento una posición política en relación con una realidad cultural que lamentablemente no está a disposición del público

es chillida leku la interpelación que mantuvimos que yo creo que aportó datos interesantes en relación con la actuación

el planteamiento que el gobierno hace en relación con el museo el gobierno pidió discreción

de ver que hay seriedad en este planteamiento

interpelación desde luego a la señora uriarte nosotros presentamos esta moción con el fin de no hacer otra cosa que seguir avanzando y que seguir en la medida de lo posible

al gobierno a que avance también en algo que es un fin loable que es un fin necesario que es un fin imprescindible para

vasca en relación con esta cuestión y yo creo que ahí están las cuestiones

dos cosas esenciales también el interés público por chillida leku y el proceso de negociación que se está abordando

discreción en la que no vamos a interferir pero dentro de lo que es parece una activa en relación con esas cuestiones nosotros a raíz de eso hemos planteado una moción la moción dice lo siguiente el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que junto con la diputación foral de gipuzkoa acuerde

y asumido por las instituciones públicas que permita la reapertura del museo mediante una fórmula que garantice su viabilidad económica y de gestión yo creo que es algo normal

por lo menos del gobierno vasco que está implicado en los mismos

con lo referente al mantenimiento del espíritu que guió al artista en la creación de ese espacio museístico

a las instituciones implicadas en la negociación a respetar el carácter monográfico del espacio la unidad permanente de la colección en los actuales terrenos y acordar

en el legado de eduardo chillida esta es una cuestión de la que ya hemos hablado forma parte de uno de los elementos

de las pretensiones legítimas y yo creo que desde mi punto de vista y desde el punto de vista del grupo popular fundamentadas

de la familia chillida y en ese sentido presentábamos esa moción los grupos

de una enmienda de transacción que va a ser la que va a salir aprobada puesto

y el grupo eh bildu que sí que nos puede parecer a nosotros un avance en relación con planteamientos anteriores

o por lo menos que sí que fija la posición no tanto un avance porque en la legislatura pasada alguno de esos grupos votaron lo que yo acabo de leer pero bueno

insuficiente en relación con lo que plantea el grupo popular con lo que plantea esta moción en relación con el museo chillida leku con las necesidades y con la responsabilidad de la familia chillida en legado

pero en el convencimiento de que estamos trabajando en este parlamento por uno de los elementos esenciales uno de los elementos claves

lehendakari nosotros compartiendo lo que planteaba el grupo popular registramos una enmienda en la que nos queríamos dirigir

vasco para que sea él quien lidere este tema que a nosotros nos parece de gran importancia y por eso proponíamos en nuestra enmienda instar directamente

y en ninguna otra institución sino al gobierno vasco para que realice todos los esfuerzos necesarios para tratar de lograr un acuerdo razonable con la fundación

en un plazo razonable a través de una fórmula que garantice su sostenibilidad y su viabilidad económica y de gestión creo que esto podemos compartirlo todos los grupos de la cámara y en el segundo de los puntos proponíamos instar a las instituciones implicadas en esa negociación que pueda darse en el futuro acordar por un lado la responsabilidad de la familia sobre el legado

respetar el carácter monográfico del espacio y la unidad permanente de la colección en los actuales terrenos y respetar en todo caso el proyecto original y el espíritu

y puso en marcha evitando en cualquier caso desvirtuarlo lo cierto es que sobre la cuestión debatimos largo y tendido durante la pasada legislatura y

años después el museo sigue cerrado y esto es lo que deberíamos digamos entre todos los grupos y con el gobierno vasco a la cabeza tratar de corregir creo que ese sería

de upyd hemos visto la enmienda transaccional que han firmado el resto de grupos y a nosotros nos parece que es insuficiente que se queda corta

todo es correcto todo lo que aparece ahí está bien pero nos parece que es insuficiente y que se queda corta falta la referencia a la necesidad en nuestra opinión de acordar la responsabilidad de la familia sobre el legado

que obviamente los grupos que han firmado esta transaccional han preferido

en este punto habría que recordar que la consejera socialista del gobierno anterior al menos públicamente dijo que defendía también esta condición y que le parecía razonable acordar la responsabilidad de la familia sobre el legado de eduardo chillida habrá que ver si efectivamente ahora el grupo socialista mantiene esa posición

y en todo caso y en este caso como en tantos otros quizás en todos los demás lo importante son

más que las palabras o incluso más que las transaccionales que aquí se firmen y se acuerden y se aprueben y sirvan para instar a realizar determinados trabajos al gobierno vasco veremos qué es lo que ocurre en el futuro lo cierto es que

chillida anunció el cierre definitivo del museo tras varios meses de negociaciones con las instituciones vascas y lo cierto también es que la familia exigió vino exigiendo

tres condiciones a las instituciones con las que ya digo que negoció por un lado que se garantizara la unidad permanente de la colección en los terrenos actuales

con derecho a veto sobre las decisiones de este órgano o al menos con capacidad decisoria evidentemente esto habría que concretarlo a nosotros a nosotros estas exigencias nos parecían y nos siguen pareciendo razonables

analizadas cada una de ellas nos parecen condiciones razonables y en todo caso evidentemente la familia está en su derecho de plantear las condiciones

también tiene lógicamente el gobierno la legitimidad para aceptar todas ellas o ninguna pero nosotros en todo caso queremos pedirle al gobierno que tenga en cuenta estas condiciones porque nos parecen razonables lo cierto es que en el pasado la familia chillida afirmó que

cuestionan cuestionaron en su momento entre otras cosas el carácter monográfico del museo que es una de las bases fundamentales del mismo y que como tal ha sido conocido y apreciado

hace algunos años no ahora pero sí hace algunos

fin habría habido una especie de choque entre distintas instituciones

una falta de claridad no solamente que no estuvieran de acuerdo en algunas cuestiones sino que a la hora de realizar declaraciones públicas parecía que había contradicciones en fin todo esto pensamos nosotros que no debería repetirse en el futuro en el presente y en el futuro

negociación que haya diálogo es evidente y lógico que cada parte defienda sus propios intereses pero que haya un diálogo

la señora consejera del gobierno socialista anterior insistía en que se admitían las tres condiciones esto es lo que venía diciendo la consejera el respeto a la configuración del museo el mantenimiento de su carácter monográfico y la presencia con derecho a veto de la familia en el futuro

no llegábamos a entender como no era posible un acuerdo y desde luego mucho menos no entendíamos como en declaraciones públicas se producía ese choque por el contrario los herederos del artista exigían incluso un compromiso escrito que recogiera

exigencias para que luego no pudiera haber ningún tipo de duda sobre cuál era el alcance del acuerdo por lo tanto discreción en las negociaciones evidentemente sí

de las partes esto es lo que nosotros pedimos en fin ya digo que pueden existir cuestiones que separen a ambas partes pero creo que el diálogo y la negociación deberían ser en todo caso sinceros la consecuencia de aquel desencuentro y del impasse posterior que creo que se mantiene a día de hoy es

el museo suspendió no solamente sus actividades de cara al público sino cualquier tipo de actividad nosotros presentamos ya en su momento varias iniciativas sobre la cuestión para decirles a las instituciones que debían hacer todo lo posible para impedir el cierre del museo y posteriormente para decirles y explicarles que debían ser ellas quienes dieran el primer paso para retomar las negociaciones con la familia y ahora les queremos exigir o pedir nuevamente que no olviden algo que

y sobre todo en nuestra opinión lo más importante que nos interesa a todos que el museo chillida leku abra sus puertas por lo que representa y por lo que nos aportó y lo que nos aportaría cada cual debe asumir su responsabilidad evidentemente pero que las instituciones hagan al menos todo lo posible obviamente

razonables para que este museo vuelva a abrirse es lo que nosotros defendemos con nuestra enmienda y que se cumplan esas tres condiciones planteadas por la familia que a nosotros nos parecen en fin condiciones perfectamente razonables luego

quienes negocien y concreten todo esto pero creo que la obligación del parlamento o al menos lo que nosotros querríamos es dar ese

para que los actuales representantes institucionales se vean interpelados se vean obligados se vean presionados digamos a asumir la responsabilidad que les toca

pueda cuanto antes reabrirse debemos tener conciencia de la extraordinaria importancia que tiene este museo para los ciudadanos de san sebastián de gipuzkoa de euskadi y del mundo nosotros pedimos a las instituciones más compromiso que pasen de las palabras a los hechos

que los museos y especialmente este museo tienen una rentabilidad que va mucho más allá de la económica tienen una responsabilidad social y cultural

olvidar al revés hay que tenerlo presente por lo tanto termino subrayando y recordando que el valor público de chillida leku es enorme como patrimonio cultural y como activo económico turístico

que se trata de un centro fundamental para el estudio de la obra de uno de los escultores más importantes y coherentes

de todos nosotros tenemos en euskadi más de cien museos quizás no podamos permitirnos tener tantos en tan poco espacio pero es evidente en nuestra opinión que no podemos permitirnos el lujo de mantener cerrado

se ha discutido sobre este tema en la pasada legislatura

y es un tema importante que tenemos por resolver por eso estamos hoy aquí quizás un poco

la consejera anunció hace poco que iniciaba negociaciones sobre este tema entonces yo creo que el momento es dentro de un par de meses ver cómo está el asunto

que se avance eso hará este grupo cuando pase un tiempo prudente para que los trabajos puedan tener lugar lo primero que tengo que decir es que el museo es excepcional es un museo de una gran belleza todos los que lo hemos visitado creo que podemos estar de acuerdo con ello tanto por la ubicación

museo chillida leku es un gran museo y me parece que es muy difícil aceptar que permanezca cerrado

enraizado en lo vasco no debería de dejarse al albur de

que no son muy razonables sino que se debería de seguir la senda que nos lleve a todos a que al público ese museo por eso deseamos que salga bien la negociación exigimos a las instituciones encabezando

que se impliquen fuertemente en ellas desde la responsabilidad del cuidado del dinero público de la decisión

sobre el museo que corresponde a quién tenga mayoría en la toma de la propiedad del museo llegado el caso

generosidad para que este museo pueda abrirse yo quiero recordar aquí me parece muy procedentes las palabras de susana chillida hija

en la universidad complutense en la facultad de filosofía con motivo del décimo aniversario

de la muerte de su padre del artista eduardo chillida dijo recordando palabras de chillida que lo que es de uno casi no es de nadie

este mensaje atraviesa siempre la obra de cualquier artista cuando deja de

y hay un ejemplo un poco extremo de esto en el cartero de neruda cuando

en boca del personaje principal del cartero que la poesía deja de pertenecer al autor cuando la hace y la da a conocer evidentemente

claro que existen derechos de autor y que hay que cobrar pero creo que la actitud

debe de ser la predisposición en condiciones razonables de precio y de desenvolvimiento

por el mayor número de personas posibles porque para eso la hace un artista hay que buscar un equilibrio por lo tanto que debe de pasar creemos por mantener el carácter monográfico

museo pero carácter monográfico no quiere decir que el museo sea un mausoleo en el cual no puede entrar una brizna de otro arte contemporáneo temporalmente que entren en diálogo con la obra del artista eso es

y eso no contradice el carácter monográfico sino que enriquece el funcionamiento del museo debe de estar en esa ubicación porque como decía es no solo una ubicación hermosa sino adecuada

porque fue diseñada por el propio artista y a mí me parece hermosa

dialogan y eso se percibe de una forma muy intuitiva tiene que tener viabilidad económica el museo tiene que ser sostenible claro

no estamos de acuerdo y no dijo nunca el gobierno anterior y dudo que dijera

que admitiera el derecho a veto precisamente

en las decisiones una vez que se reorganiza el museo se reestructura se logra un modelo de museo viable y de futuro

que aumente su atractivo de tal manera que atraiga visitantes porque hay que recordar que

fue bajando y también el número de ingresos a partir de ahí la familia

con las instituciones para buscar una solución pues bien esa solución se buscó hace dos legislaturas

escrito la legislatura pasada con gran esfuerzo por parte de todos se llegó

que cuando faltaba concretar los detalles en un contrato fue roto unilateralmente por la familia de forma sorpresiva como reconocieron una nota de prensa para expresar claramente la situación

nota de prensa conjunta la diputación foral de gipuzkoa el gobierno vasco anterior con gran pesar porque se había llegado a un acuerdo en lo económico y en las condiciones de desenvolvimiento

sobre las decisiones quien diga eso miente otra cosa es que sí se dejaba

la participación en el patronato sin voto de calidad es decir sin veto e incluso se le daban ventajas aparte del justiprecio

algunas ventajas de participación en el porcentaje por el merchandising y en fin

otras ventajas quiero recordar también que

a punto de cerrar y eso también aquí tenemos que tenerlo en cuenta los criterios de fomento de la cultura

a todo el sector cada uno en su medida y con la urgencia que corresponda pero no debemos de olvidarnos de otros museos que están en dificultades en cuanto a la participación institucional el gobierno vasco tiene la responsabilidad de liderar es

que esté abierto la diputación foral de gipuzkoa debe de participar también intensamente y colaborar pero el ayuntamiento de hernani tiene algo qué decir normalmente

las instituciones culturales relevantes que están en el municipio el ayuntamiento

está presente en el balenciaga el de bilbao está presente por lo menos

cada ayuntamiento participa en la medida de sus posibilidades pero participa impulsando y ayudando con intervenciones incluso urbanísticas si fuera necesario

el fomento de la cultura si tienen sobre todo un museo de esta entidad en su territorio y el gobierno de españa yo quiero recordar que en dos mil doce cuando estuvo el ministro wert con motivo

dijo que textualmente pondré todo lo que esté en mi mano para intentar revitalizar este proyecto

un proyecto tan importante que por ser vasco es español y que recibe del conjunto de españa el setenta y tres por ciento de los visitantes concretamente de euskadi el catorce

creo que el esfuerzo que hizo el gobierno vasco anterior y el anterior para llegar a un acuerdo que se sustanció en

a firmar y que luego rompió en fin probablemente porque no aceptaba no tener derecho de veto y por expectativas económicas que variaron en el último momento pero ese esfuerzo tiene que tener continuidad ahora

el gobierno vasco consejera tiene la responsabilidad de abordar este asunto

el periodo de sesiones porque es un asunto muy importante a ver a cuántas

ha traído usted al debate de este proyecto qué ha puesto sobre la mesa esperemos que un

no necesite más tiempo para enviarlo a este parlamento como ha dicho antes de este debate hubiera sido bueno tenerlo para conocer cómo va a desarrollar en principio la negociación pero en cualquier caso de entrada tiene usted la confianza durante estos dos meses para hacer esa negociación y visto

de alguna de las partes anterior para hacerlo de una forma abierta porque

con propietarios públicos privados y socios

pero creo que tiene que ser rápida intensa liderando las instituciones

fijadas pero yo sí quisiera no sé hacer una y vuelvo a decir

del respeto a esa discreción y desde luego

por buen camino porque los criterios están fijados el otro día la consejera ya lo dijo en relación con qué es lo que ella quiere como

la pregunta sería sobre todo al partido socialista y al partido nacionalista vasco por qué han rebajado su postura es decir

en dos mil once aprobamos un texto por unanimidad en esta cámara

que se insta a respetar el carácter monográfico del espacio bueno eso está asumido a la unidad permanente de la colección en los actuales terrenos y así mismo se decía

de eduardo chillida a modo de seguir transmitiendo con coherencia y dignidad el proyecto original en el que

en marcha esa declaración de diecinueve de octubre de dos mil once de la comisión de cultura está ahí y la votaron ustedes no me acuerdo quiénes serían los portavoces parlamentarios en aquel entonces pero se firmó y ahí se habló de eso en términos generales porque efectivamente eso habría que acordarlo eso tendría que formar parte de la negociación

del planteamiento la enmienda de transacción que ustedes plantean

yo voy a votar a favor de la enmienda de transacción me parece absolutamente insuficiente pero yo quiero que el parlamento vasco

vamos a hacer ese planteamiento en positivo y ser proactivos

en las gestiones iniciadas con la fundación chillida belzunze al objeto de concretar un modelo que garantice su viabilidad económica

respetando en cualquier caso el carácter monográfico del espacio y la unidad permanente

pero falta eso falta lo que ustedes también decían el diecinueve de octubre de dos mil once y que ahora no dicen pues las causas que ustedes entienden pero que nosotros consideramos

en relación con la responsabilidad de la familia sobre el legado de eduardo chillida parece que tratan de minusvalorarla y ya tratan de decir veto

planteamientos museísticos en otros planteamientos sobre colecciones que ahora forman parte que están en manos públicas pero que tienen esa función también pública de cara o sea que en ese sentido esas responsabilidades

que se redacten y que se acuerden y se gestionen con coherencia y en favor del mantenimiento de la colección o en favor del mantenimiento del legado o en favor del mantenimiento del mantenimiento del museo como es en este caso

no voy a entrar en discusión yo hago esa pregunta sobre por qué se cambio de postura pero en cualquier caso vuelvo a decir que quiero se proactivo o positivo o constructivo en relación con este tema y vamos a seguir avanzando tengo que decir también que el señor reyes ha hecho una interpretación

un poco curiosa desde nuestro punto de vista del carácter monográfico del museo nosotros

de la entrada de un museo que entre con otros artistas en diálogo

hemos entendido siempre se lo hemos oído a los representantes

hemos entendido en la concepción de ese museo que ese museo el diálogo lo tienen con el entorno y lo tiene con el visitante con el entorno porque es en sí mismo

y de entorno y de campo y de

y quién va a verlo el visitante pero eso es una cosa que ahí está

por la época anterior la verdad la época de gestión anterior del gobierno vasco en relación con esta materia fue absolutamente insatisfactoria pero bueno vamos a entender

por lo menos lo iremos analizando en función de los pasos que dé el gobierno vasco muchas gracias eskerrik asko barrio jauna maneiro jauna mistoa upyd

sí gracias bueno decía el señor reyes que este gobierno ha reiniciado

chillida y que por lo tanto necesita tiempo y que sobre esta cuestión deberemos debatir en los próximos meses y es cierto pero también es cierto que este gobierno tomó posesión hace año y medio y que al parecer hasta hace muy poco tiempo

para intentar reabrir el museo si no es así celebro celebro que el gobierno tomará en consideración este asunto y en cuanto llegará al poder

fue una acierto ahora de lo que se trata es que efectivamente estas negociaciones que evidentemente tienen que ser abiertas y el gobierno tiene la obligación de velar por el interés

y qué es lo que ocurre señor reyes yo creo que no he mentido estuve muy atento a esos debates

perfectamente y efectivamente la consejera de cultura la consejera de cultura dijo insistentemente que se aceptaban las tres

y que fueron unos flecos lo que hicieron que el acuerdo no fuera posible si aceptaba

quiere decir que estaba de acuerdo con la participación de la familia en ese patronato

o llámelo usted como quiera pero aceptaba las tres condiciones y luego fue cuando se señaló aquello de que había habido diferencias económicas

negó la familia chillida negó y la familia chillida lo que dijo fue además de pedir un compromiso por escrito

no aceptó lo que dijeron fue que las instituciones cuestionan entre otras cosas el carácter monográfico del museo y escuchándole hoy a usted

porque efectivamente si el carácter monográfico del museo

que ese carácter monográfico no se respetaría en fin y en todo caso en su transaccional no han incorporado este asunto la necesidad de acordar la responsabilidad de la familia sobre el legado de eduardo chillida esto es cierto

fundamental y quizás única entre ambas propuestas nosotros lo incluimos el señor reyes ha dicho que el gobierno socialista aceptaba también esa condición así lo he entendido yo pero sin embargo no lo han incluido en la transaccional

insuficiente y se queda corta en todo caso

y no tanto las palabras y lo cierto es que el gobierno socialista anterior no estuvo a la altura y de momento el gobierno actual tampoco o al menos

el objetivo este de reabrir cuanto antes este museo iremos viendo qué es lo que ocurre en el futuro pero en nuestra opinión

ni un gobierno ni el anterior ni este han estado a la altura de lo que se exigía y para terminar

que muchos de ustedes insistan tanto en esto del uso del dinero público cuando

el uso del dinero público no parece que sea tan importante

para san mames o diez millónes de euros para anoeta o catorce millónes de euros para el buesa arena

parece que nadie cuestiona nada nadie cuestiona el uso del dinero público

al menos en relación con la aportación de los diez millónes de euros del gobierno para la remodelación del campo de anoeta veremos a ver si los grupos son tan en fin

con el uso del dinero público a nosotros nos da pena que en una cuestión tan importante como esta de extraordinaria trascendencia se insista tanto en esta cuestión por supuesto que hay que utilizar bien el dinero público por supuesto que sí pero llama la atención que en otros temas ustedes no hablen de esto y sin embargo cuando estemos hablando de este

y de este extraordinario museo entonces sí hay que hacer un uso correcto del dinero público es ciertamente lamentable en todo caso como el señor
barrio yo también votaré a favor de esa transaccional aunque nos parezca insuficiente eskerrik asko maneiro jauna

señor maneiro vive en la demagogia espero que no pueda vivir de la demagogia porque

ha dicho que en el gobierno vasco anterior se habían aprobado las tres condiciones no se ha atrevido a decir cuáles no ha podido no no se ha atrevido a repetir cuáles yo le he cuestionado el derecho de veto y no se ha atrevido a citarlo porque ya no está seguro mire le voy a decir porque es mentira que se hubiera admitido el derecho de veto cuando se rompieron

el gobierno vasco y la diputación foral de gipuzkoa hicieron una nota de prensa por lo tanto pública conjunta decían que les había sorprendido la forma desleal de anunciar la decisión y añadían lo último que esperábamos es una ruptura de las negociaciones

estaban trabajando en los detalles menores del acuerdo en los detalles menores del acuerdo un acuerdo efectivamente que no incluía el derecho de veto porque

unilateral dice que las instituciones vascas dice para ella no cumplen o no pueden cumplir los compromisos

yo no sé cuáles eran los compromisos del dos mil nueve en fin de un gobierno anterior al socialista pero la referencia no habla de los compromisos del acuerdo que ya estaba hecho en el dos mil once está hablando del dos mil nueve y lo dice la familia en su nota de prensa el derecho a veto no fue aceptado por el gobierno socialista sí la participación en el patronato sí

el que tuviera una participación en el merchandising

en algunas decisiones un arbitraje si fuera necesario respecto

bien no hemos rebajado les respondo a los dos señor barrio y señor maneiro al firmar

hemos rebajado la postura que mantenemos mantenemos el carácter monográfico

lo que significa claro concepto monográfico sí porque igual se van al diccionario y miran la literalidad de monográfico oiga es que en los museos un museo monográfico es aquel que tiene la obra de un autor o

que no tiene por que ser de un solo autor pero siendo monográfico tiene exposiciones temporales de otros autores que entran en diálogo dice la gente de la cultura con esa obra temporales tal y eso enriquece y eso atrae visitantes pero es monográfico es

que no se mueve de allí que es íntegra y que tiene una actividad museística moderna

llega a decir tonterías como las que acaban de decir monográfico sí en el mismo sitio también

ahora bien respeto al veto no entiendo cómo ambos mantienen

la capacidad de decisión sobre la organización del museo sobre la evolución de la actividad del museo en el futuro respetando las condiciones

pero lo que es la estructura del museo necesaria para hacerlo eficaz en su funcionamiento la programación de ese

cómo dicen que en eso tiene que tener derecho de veto alguien

o no va a tener la mayoría en la propiedad del museo y mucho menos entiendo que lo defiendan dos grupos parlamentarios cuando se trata de dinero público público que va a estar de distintas instituciones ojalá que va a estar en ese patronato

cómo es posible una cosa es el mantener la referencia y la consulta y algún tipo de condicional y otra cosa es lo que pedía la familia que es el derecho de veto de calidad y en la misma nota prensa

la familia se reserva el veto en lo que afecta a la salvaguarda de la obra voto de calidad oiga puede mire pues igual eso no puede ser

que defienden el interés común defiendan antes la opinión muy respetable de los herederos

por encima de la decisión de las instituciones que pueden llegar a gobernar un museo o a cogobernar eso me parece inadmisible y señor barrio yo ya entiendo que últimamente usted sale aquí nos cuenta sus cosas explica sobrevuela ya que qué hace el gobierno de españa porque este es un museo español que qué hace el gobierno de españa dos años después de que el ministro se comprometiera a hacer algo pero dónde está

habrá que exigir a todas las instituciones a todas que se impliquen porque está en otros museos vascos por qué no participa en este también al menos en el intento de solución

por qué no puede estar ahí y finalmente sigo preguntando

el ayuntamiento de hernani porque si queremos poner en valor el patrimonio cultural que tenemos tendrán que estar todas las instituciones relacionadas al menos sentadas para hablar e impulsar una solución y eso tiene que liderarlo el gobierno vasco y lo demandaremos con claridad rigor energía ánimo constructivo sí pero exigiendo la resolución antes de que acabe este periodo de sesiones al gobierno vasco que tiene que aplicarse y en ello tiene

he intentado ver alguna aportación en todo lo que ha dicho pero por más que me he esforzado no he logrado ver nuevas aportaciones el suyo ha sido un intento fallido de justificar por qué ha traído su propuesta porque nuestra opinión no tenía ningún sentido después de haber escuchado a la respuesta a su interpelación de la señora consejera

postura le voy a leer nuestra enmienda porque queda clara

el parlamento vasco insta al gobierno a que junto con la diputación foral de gipuzkoa siga avanzando en las gestiones iniciadas con la fundación chillida al objeto de concretar el modelo de museo que pueda resultar su viabilidad y la fórmula económica que más pueda encajar para el interés de todas las partes negociadoras

por tanto ni siquiera ese intento de falsear la realidad le sirve para justificar su actitud de intentar sembrar dudas e interferir en las negociaciones

su única aportación si estamos de acuerdo en que la discreción es una condición imprescindible

negociar acordar y veamos si se llega a un acuerdo y entonces únicamente entonces será la hora de las valoraciones positivas o negativas

presidenta en este caso hablamos de los actos vandálicos

el pasado día tres de marzo en bilbao pero no solo de eso sino también de la actuación del departamento de seguridad del gobierno vasco para

de la propia responsabilidad de la consejera de seguridad en relación a la forma en que se trató o no se trató de atajar esos actos violentos absolutamente inaceptables y condenables en una sociedad

nosotros interpelamos a la consejera hace quince días y a partir de ahí presentamos esta moción que se acumula con otras dos iniciativas presentadas anteriormente por el grupo popular y por el grupo socialista

parlamento por un lado lo que cualquier parlamento democrático aprobaría por unanimidad y es que condene de manera contundente los actos vandálicos perpetrados por grupos de violentos el pasado día tres de marzo en bilbao

solidarizarnos con las personas afectadas con los comerciantes con los hosteleros con los trabajadores con los clientes con los viandantes que pasaban por allí

y queríamos también que este parlamento se comprometiera a realizar

al gobierno para ayudar también a impedir que tales hechos violentos puedan volver a repetirse y finalmente pedíamos queríamos pedir con esa moción

a adoptar las medidas necesarias para que tales hechos violentos no puedan volver a repetirse en el futuro

y la seguridad del conjunto de los ciudadanos de euskadi el departamento de seguridad no estuvo a la altura la consejera de seguridad no estuvo a la altura y posteriormente no hizo ningún tipo de autocrítica para corregir la actuación aquel día tres de marzo nosotros nos remitimos a los hechos a lo que ocurrió a lo que terminó ocurriendo a lo que hemos visto a los videos a los que hemos tenido acceso

en fin a las reclamaciones de los viandantes que pasaban por allí de los comerciantes y de determinados sindicatos de la ertzaintza o incluso de los propios agentes de la ertzaintza

concluimos algo que creo que todos tenemos claro y es que el departamento de seguridad no estuvo a la altura y por lo tanto en hechos posteriores cuando vuelvan a ocurrir cosas parecidas debe actuar la ertzaintza de otro modo precisamente para que ocurran cosas

por lo tanto pedimos por lo menos al departamento un mínimo de autocrítica que no hemos podido atisbar durante las semanas

la consejera de seguridad insistía en que había tres objetivos tenía tres objetivos el departamento el buen desarrollo del foro económico

parece ser que estos dos objetivos pueden ser considerados como aceptados se lograron pero sin embargo hay un tercer objetivo que en

que es el de garantizar la seguridad de los ciudadanos no se logró y por lo tanto no tiene sentido

decir que el dispositivo funcionó y decir que el dispositivo funcionó porque evitó que la algarada se extendiera a toda la ciudad y la ciudad acabara en llamas hombre algo más habría que exigir al gobierno además de que bilbao no acabará pasto de las llamas por lo tanto es obvio en nuestra opinión que no se garantizó la seguridad

la propia consejera de seguridad llama la atención la impunidad absoluta con la que estos violentos actuaron el día tres de marzo la labor de la ertzaintza ha sido

y la labor del departamento de seguridad por todos o casi todos los partidos políticos democráticos ha sido criticada por todos los sindicatos ha sido criticada por los propios agentes de la policía vasca criticó el dispositivo policial incluso pidió el cese del director

se ha hablado y así se dijo en la comisión en la que compareció este sindicato de caos organizativo de falta de respuesta

no adecuado de ciudadanos desprotegidos de medidas desacertadas se dijo que no se intentó y se dijo que el material utilizado fue e insuficiente se dijo que hubo órdenes de no utilizar los lanzadores y las escopetas se dijo que la mesa de crisis no actuó correctamente y que

destrozos e incidentes se dijo y así ha sido creo que es un hecho también

ha sido dañada que los agentes empleados fueron insuficientes

que hubo un grave error de planificación que se encontraron como pollos sin cabeza y que así no se puede trabajar todo esto es lo que nos dijeron esto es lo que nosotros vimos y es lo que pudimos observar por eso traemos a debate cuestión para que este parlamento condene estos actos absolutamente inaceptables para que se solidarice con los ciudadanos afectados también con los

heridos y para exigir al departamento de seguridad que en el futuro

actúe mejor de lo que ha hecho porque ciertamente su actuación fue absolutamente lamentable hemos llegado a una transaccional entre el grupo popular el grupo socialista y upyd

el día tres de marzo y que rechace la violencia callejera desatada por quienes no asumen los métodos democráticos y pacíficos como medio de protesta queremos que este parlamento muestre su solidaridad con los vecinos con los trabajadores

afectados queremos respaldar a los agentes de la policía vasca y queremos también solidarizarnos con aquellos que resultaron heridos

al departamento de seguridad a que analice los errores cometidos en la planificación y dirección del operativo

para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a producirse creo que esta es una transaccional

que resume perfectamente aquello que nosotros consideramos necesario en esta cuestión solamente

exigir nuevamente la dimisión de la consejera de seguridad pero lo cierto es que eso es algo que únicamente upyd ha venido defendiendo pensamos que la cúpula del departamento está incapacitada para dirigir correctamente

aquí pedimos nuevamente su dimisión más allá de que haya un acuerdo con

foro global españa dos mil catorce y en el museo guggenheim se dieron cita diferentes representantes de organismos económicos internacionales

esta reunión y lo que representan la mayoría de los convocados suscitó toda clase de controversias y debates algunos de ellos sustanciado en esta misma cámara

rechazaron con diferentes acciones lo que representaba la mayoría de los presentes y sobre todo su postura ante la crisis las medidas para salir de ella y además su servicio a los intereses del capital financiero el rechazo de una parte de la sociedad vasca se concretó básicamente en dos formas de ejercer la protesta la inmensa mayoría de quienes se manifestaron

pero de la última surgieron grupos de encapuchados que aprovecharon el derecho a manifestarse para atacar los bienes públicos y privados y para generar un ambiente de inseguridad entre la población que trabajaba o transitaba por los lugares por donde transcurría la manifestación

derechos ciudadanos hubo personas que se vieron agredidas amedrentadas y acosadas por los violentos

el lunes en la comisión de seguridad un ertzaina que participó en el operativo nos contó

por eso el grupo socialista presentó esta iniciativa nada más conocerse los graves incidentes ocurridos en bilbao ese día tres de marzo con motivo

la presentamos por el procedimiento de urgencia aunque no fue admitida pero lo hacíamos por la alarma social que estos hechos provocaron en la ciudadanía dada la gravedad que revistieron

se encargaron de destacar este parlamento por tanto no podía quedarse al margen de estos hechos que para mucha gente parecían retrotraernos a los peores tiempos de la violencia callejera

a la acción terrorista de eta por eso porque tenemos grabados en nuestra memoria los daños causados a nuestras libertades por la violencia callejera en este país es por lo que no estamos dispuestos a que vuelva a reproducirse y se recicle aprovechándose de cualquier tipo de excusas este país

a sembrar el terror en nuestras calles no necesitamos ni salvapatrias ni salvaobreros no necesitamos justicieros

que nadie les ha asignado no queremos reventadores de manifestaciones

muchos socialistas vascos participamos en las protestas contra las políticas antisociales que promueven los poderes económicos y financieros internacionales por eso desde la legitimidad que nos da nuestra posición socialista de izquierda pero también democrática décimos que luchar contra esas políticas resulta absolutamente incompatible

amedrentando a los ciudadanos por poner un ejemplo nos vamos a referir al caso de las mareas blancas en madrid no hizo falta en madrid destrozar ningún mobiliario

ni ningún bien privado lo que se hizo de manera decidida constante y tenaz

que no se privaticen diferentes hospitales de la sanidad pública madrileña y esto que valió para madrid

entre otras razones porque no tenemos la más mínima constancia de que la violencia haya sido un factor de avance social más bien ha sido todo lo contrario

conviene recordar que el día anterior a los altercados violentos de bilbao

ya se habían manifestado contra las políticas de recortes sociales

y financieros internacionales y de esa manifestación no surgieron encapuchados que sembraran el caos y el miedo por la ciudad entre otras razones porque esas centrales sindicales

ni mucho menos están dispuestos a hacer causa común con quienes siembran la violencia por las calles como según aseguró el señor gabilondo en comparecencia en esta cámara podía haber hecho

liderada por las centrales sindicales ela y lab acciones violentas como la de bilbao

simplemente nos empobrecen más a todos y además de empobrecernos pueden servir de excusa a los partidarios de la mano dura para arremeter contra las libertades públicas a los socialistas

que de bilbao y de euskadi pudo trascender a raíz de estos hechos pero nos preocupa mucho más la situación de inseguridad que vivieron muchos ciudadanos y ciudadanas de bilbao

y nos preocupa en extremo que estas personas no se sintieran protegidas por la policía vasca como afirmaba sindical en su comparecencia parlamentaria este nos contaba

de la cual salían y entraban violentos encapuchados ciudadanos y ciudadanas se acercaban a ellos para manifestarles que habían sido violentados de una forma u otra y lo que es más grave

de no interferir en la manifestación como ya he comentado el pasado lunes tuvimos ocasión de debatir con los máximos responsables del departamento de seguridad

el día tres de marzo la conclusión a la que llegamos es que la planificación las directrices recibidas por los agentes y los medios empleados no fueron los adecuados a pesar de que la consejera se empeñe en decir que se hizo lo correcto y que las consecuencias eran inevitables dadas las circunstancias pensamos que el departamento de seguridad debe reflexionar y rectificar su política de seguridad si es que realmente la tiene dos evidencias

una los destrozos y la conculcación de derechos de la ciudadanía que no pueden ser tenidos a cuenta de inventario para otras ocasiones y la otra que el grupo que en esta cámara

que sigue sin condenar los asesinatos y otras agresiones sufridas por los agentes a lo largo de todos estos años haya coincidido con el departamento de seguridad el operativo del tres de marzo en bilbao este simple hecho consideramos que sería motivo más que suficiente para que el gobierno reflexionara y rectificara que nadie manipule lo que estamos planteando el gruposocialista

en ningún caso pedimos medidas desproporcionadas en el legítimo uso de la fuerza por parte de la policía ante hechos como el que estamos tratando exigimos de los responsables de la ertzantza directrices

por eso hemos firmado una transacción en la que se incorpora una llamada al departamento de seguridad al análisis de los errores

de medidas para que hechos de esta naturaleza no se repitan

con la enmienda firmada queremos condenar los destrozos causados por las minorías violentas y expresar nuestra solidaridad con los comerciantes trabajadores y vecinos afectados por estas acciones queremos rechazar

ni los métodos democráticos y recordar al mismo tiempo que las acciones vandálicas son responsabilidad exclusiva de quienes las practican y les dan cobertura cuestión esta de especial importancia teniendo en cuenta el aprovechamiento que el gobierno de la derecha en españa trata de hacer de este vandalismo callejero

criminalizar o intentar restringir las protestas sociales queremos también

que tuvieron que enfrentarse a los incidentes en condiciones muy difícil para ellos

y expresar al mismo tiempo la solidaridad con los agentes que resultaron heridos y contusionados porque pensamos como partido democrático que hay que expresar

y los derechos de la ciudadanía en cumplimiento de la legalidad y sobre todo cuando la consejera de seguridad de asumir las responsabilidades que le corresponden por los graves incidentes pretende escurrir el bulto acosándonos a quienes le criticamos de querer desprestigiar a la ertzaintza y de manchar su nombres pues no los socialistas

a todos como ya se ha dicho aquí efectivamente el pasado tres de marzo se celebraba en bilbao

a bilbao y por ende a euskadi dentro del mapa mundial el foro impulsado por el partido popular del país vasco y organizado por el gobierno de españa en colaboración con las instituciones vascas convertía a bilbao y a euskadi en el centro de la economía mundial el foro global spain dos mil catorce una cumbre al más alto nivel político y económico congregó

institucional y empresarial el foro el más relevante de los de este tipo celebrado nunca en euskadi fue un éxito de asistencia y de organización

de más de medio centenar de medios de comunicación para cubrirlo queremos reivindicar eventos como este queremos que eventos como este foro se sigan potenciando y se celebren en euskadi porque son fuente de oportunidades y de proyección internacional demostrar las potencialidades

la verdad es que algunos partidos no acaban de definir si la celebración del foro en euskadi era una noticia positiva o no

que era una oportunidad para aprender y ganar en competitividad una oportunidad para el desarrollo económico para crear empleos y generar riqueza otros representantes en otras instituciones gobernadas también por el partido nacionalista vasco señalaban que el foro no era más que una operación de marketing y que si las instituciones vascas acudían era solo porque habían sido invitadas el foro dispuso en principio del mayor dispositivo de seguridad que se recuerda en euskadi casi mil dispositivos entre

pero no sirvió para frenar a los violentos que protestaban por la celebración de dicho evento el escenario en bilbao el tres de marzo fue dantesco porque una minoría de violentos

contra todo lo que encontraban a su paso grupos organizados de vándalos se dedicaron a sembrar el caos en bilbao utilizando para su ataque todo tipo de elementos papeleras piedras tapas de alcantarilla petardos tuercas cócteles molotov hacia tiempo que en la villa no se recordaba una ataque tan violento lunas destrozadas persianas en las que se prendió fuego un video de un escaparate destrozado imágenes de un pasado

se niegan a abandonar causaron así daños en comercios en bancos en establecimientos hoteleros no se libraron ni marquesinas ni contenedores incluso arbolés concretamente fueron atacadas veintiuno entidades bancarias diecinueve comercios y bares y un hotel con un resultado cuya cuantía asciende a cien mil euros aunque algunos hayan tratado

a iniciativa del grupo popular en el ayuntamiento de bilbao en el pleno celebrado esta misma semana se ha acordado que sea el ayuntamiento el que se persone en los procesos judiciales que se abran para la reclamación de los daños causados como decíamos los ataques a escaparates

y los comerciantes y los viandantes sintieron miedo ante esta avalancha de ataques sin que hubiera presencia policial para atajar los estragos

otros dos grupos queremos que este parlamento en primer lugar condene los actos violentos y los destrozos ocurridos en bilbao el día tres de marzo con motivo de la celebración del foro global

desatada por quienes no asumen como décimos los métodos democráticos y pacíficos como medio de protesta y crítica

también que muestre su solidaridad con los vecinos con los trabajadores con los comerciantes y con los hosteleros que fueron objeto en primera persona de los actos violentos

cuyos objetivos como se ha dicho aquí y porque lo dijo la consejera eran tres

sin embargo creemos que estos objetivos no se cumplieron o al menos no todos la imagen que se trasladó de bilbao puede tener consecuencias muy negativas para euskadi como destino turístico y para bilbao concretamente pero mucho más importante que esa imagen era que los comerciantes se sintieron amedrentados que la seguridad de los ciudadanos estuvo en riesgo que los derechos al trabajo y a la libre circulación no se respetaron

económico por definirla de una forma eufemística fue manifiestamente mejorable muy mejorable

es si esa actuación fue fruto de una planificación operativa diseñada de forma inadecuada o si respondió policiales del gobierno vasco que surgen de una determinada concepción policial el gobierno vasco era perfectamente consciente de la magnitud mediática nacional e internacional que tenía el evento que se celebró en bilbao

la del bilbao de la torre iberdrola la imagen de una villa rebosante de actividad de vitalidad de relevancia económica y desde luego la de un bilbao ausente de actos vandálicos

jornada no se consiguió ninguno de estos objetivos como suele ocurrir en este tipo de eventos los radicales se apoderaron de las calles y sembraron de actos violentos en la comparecencia la señora consejero dijo que los violentos no habían conseguido sus objetivos evidentemente

pero yo quiero hacer la misma pregunta retórica que hice en la comisión de verdad

señorías que los violentos no consiguieron sus objetivos de verdad lo creen así bilbao fue noticia por la quema de contenedores por la rotura de escaparates por los ataques a todo tipo de inmobiliario urbano bilbao

agravada por la deficiente actuación de quien tenía que garantizar el control de la seguridad y no lo hizo la imagen de la policía vasca fue la de un cuerpo de policía desbordado por los acontecimientos e incapaz de hacer frente y menos aún de sofocar los actos violentos que se produjeron

ante los ataques y con una actitud totalmente pasiva todos hemos conocido a través de los medios de comunicación

que demuestran que la actuación de nuestra policía fue planificada y premeditada y que respondió a directrices políticas

la imagen pública a nivel nacional e internacional de la ertzaintza quedó trastocada y fue puesta en entredicho

y su buen hacer policial forjado durante décadas de trabajo

que alterar gravemente la convivencia ciudadana el gobierno no puede convertir a la ertzaintza en una policía de museo que actúa a remolque de la comisión del delito y que llega tarde

no actúa las actuaciones conocidas a través de los medios de comunicación y a veces vividas en primera persona han sido objeto de crítica de todos los partidos políticos han sido objeto de crítica de los comerciantes de los viandantes de los afectados pero es que es más estas actuaciones

tal y como pusieron de manifiesto en esta cámara el pasado lunes pero a quien deben producir sonrojo no es a los agentes a quien debe producir sonrojo es a los responsables del departamento de seguridad

para hacer frente a un evento de esta envergadura y podían haberlo estado señorías podían haberlo estado

profesional que está a la altura de cualquier policía europeo pero para ello

por ello solicitamos el respaldo de este parlamento a los agentes de la ertzaintza por su actuación del pasado tres de marzo y nos solidarizamos especialmente con aquellos que resultaron heridos

sus agentes son personas muy preparadas pero quienes no están tan preparadas son sus dirigentes políticos y por ello

para que situaciones como la ocurrida en bilbao no vuelvan a repetirse ese

a la enmienda que hemos firmado con el partido socialista y con upyd esperamos el respaldo de esta cámara a esta enmienda porque similares propuestas han contado ya con el refrendo de otras instituciones
y como decía en el ayuntamiento de bilbao esta misma semana nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euzko abertzaleak taldearen

unos por su oposición radical al sistema otros hartos de unas políticas que imponen recortes a los gobiernos y a los ciudadanos

y mucho de interés propagandístico lo cierto es que no fueron muchos los ciudadanos que apoyaron entusiásticamente este foro ante el mismo las respuestas fueron diversas hubo quienes como el lehendakari desde la responsabilidad institucional acudieron al mismo para defender el modelo de economía productiva de euskadi y para instar desde allí

y una sociedad justa y equilibrada otros grupos optaron por llevar la protesta y la oposición a la calle de forma pacífica un total de doce manifestaciones y concentraciones habían sido convocadas legalmente para ese día en bilbao por gran número de partidos sindicatos y otro tipo de organizaciones sociales

en ese magma se produjo la actuación de personas y grupos más o menos organizados que valiéndose de la más numerosa de las manifestaciones convocadas desarrollaron una actividad violenta

actuaron con las mismas tácticas usadas por esos violentes encapuchados

violencia callejera premeditada y organizada violencia que con el objetivo de multiplicar los incidentes

provocando cuantiosos daños en bancos comercios establecimientos de hostelería y numerosos bienes públicos como baldosas bancos papeleras etcétera que supusieron pérdidas que rondan los cien mil euros y lo hicieron

como parapeto para desde allí comenzar los ataques violentos volviendo a la misma para protegerse poniendo en riesgo así no solo a los manifestantes que legítimamente expresaban su protesta

este pasado lunes pudimos comprobar en la comparecencia de la consejera de seguridad cómo actuaron estos grupos violentos saliendo y entrando de la manifestación a destrozar sus objetivos incluso pudimos comprobar

para que entrasen tras ellos a disolver la manifestación legal que pretendía realizar su recorrido con normalidad

la ertzaintza señoría por mucho que se empeñen en deformar o exagerar la realidad

y lo hizo en nuestra opinión con eficacia de una manera proporcional y responsable por mucho que se empeñen en desviarlo no era un reto sencillo

incluso recientemente en madrid gravísimos incidentes con consecuencias personales graves lesiones y hasta muertes

que se hablase del mismo no por su contenido sino por la violencia que pretendían de manera deliberada y si era necesario multiplicar y dispersar los incidentes para causar la sensación de una ciudad en llamas efectivamente de una ciudad en llamas

organizó un dispositivo como no se había organizado nunca en bilbao hasta la fecha

movilizados en un solo día el tres de marzo ciento trece vehículos de distinto tipo

la celebración del foro pero también de las legitimas manifestaciones de oposición al mismo y por supuesto que se mantuviese razonablemente la seguridad ciudadana en toda la ciudad

y a pesar de todo ello no fue posible evitar los incidentes violentos como no lo ha sido en otras ciudades en contextos similares incidentes a lo largo de la gran vía con importantes daños materiales que ya hemos detallado

incidentes que repito fueron protagonizados por grupos de personas organizados

con el objetivo de reventar la cumbre y desestabilizar la ciudad grupos organizados que no dudaron en boicotear una protesta legítima en poner en riesgo la seguridad de personas y bienes utilizando las alrededor de tres mil personas que se manifestaban en la gran vía

y escudo en el que protegerse ante esta provocación había diferentes maneras de actuar y se optó por la proporcionada y proporcional

haber entrado a disolver la manifestación con una dotación suficiente de agentes y material antidisturbios hubiera abierto otros escenarios menos deseables más imprevisibles y muy probablemente de consecuencias más graves y dramáticas se optó por una respuesta responsable

y detener hasta el día de hoy a ocho no se trató señorías de falta de medios y de previsión y mucho menos de falta de decisión inacción o no sé qué atenazamiento por hechos sucedidos en el pasado reciente la ertzaintza como llegó a decir una responsable política

una policía con la que se identifiquen y a la que respeten los ciudadanos a los que sirven cercana y próxima que se esfuerce en evitar el delito pero que sea capaz de reaccionar ante el mismo haciendo eso sí uso proporcional de la fuerza y bajo esas

y creo sinceramente que se hizo con profesionalidad y acierto los incidentes fueron graves es cierto los daños materiales importantes

como de otras muchas deberá sacar conclusiones el departamento de seguridad y adaptar sus políticas corregir los fallos detectados y mejorar los dispositivos

del plan estratégico horizonte dos mil dieciséis pero

los incidentes violentos tienen unos responsables y no son la troika

y mucho menos la ertzaintza o el departamento de seguridad por mucho que se empeñen en distorsionar la realidad

abrió sus titulares el día siguiente con la cumbre de bilbao ni por su contenido ni por los incidentes producidos los responsables

confiamos en que otros sean también identificados y detenidos en fechas próximas

a las consecuencias de los daños que causaron consciente y voluntariamente

y quería empezar con esta aclaración para que por lo menos

en este debate o participando en este debate en esta cámara sino por quien pueda verlo después quede clara cuál es la posición de eh bildu

eh bildu no comparte y no ampara sino que rechaza los incidentes que se provocaron o que se produjeron

pero no solo eso o no solo nos quedamos ahí porque creemos que tan importante como tener una posición sobre eso

es tener una lectura de contexto es entender es intentar

que a nadie le ha gustado y ese es un verbo que se ha utilizado incluso muchas veces aquí diría más que no nos parece bien

los incidentes que se produjeron en bilbao y una vez aclarado eso lo que podríamos hacer aquí es pensar en qué cosas

actuaciones políticas podemos llevar a cabo para evitar que se produzcan y probablemente ahí empiezan los disensos pero ese es realmente el debate interesante porque en el otro parece que poco recorrido hay ya

y en el terreno del debate del significado de ese contexto que no era solo una cita más o menos importante más o menos querida por según qué formaciones políticas

más de un organismo que para nosotros adolece de tres elementos claros no es democrático no es transparente y no es legítimo y estoy hablando de la troika

y la comisión europea creado para rescatar a grecia en mayo del dos mil diez y que todavía hoy a través de la figura no sé si literaria de los hombres de negro

en todo el continente europeo esa es la foto que para nosotros es indigna de verdad como lo es

que la troika encuentre cariño encuentre calor encuentre simpatía entre nosotros y nosotras porque eso es tanto

porque las medidas que se están aplicando por estos señores y por estas señoras son medidas que están agrediendo de manera directa y fundamental los derechos de la ciudadanía

con la cita clara de rechazo a cualquier actuación violenta moviéndonos siempre desde el marco institucional hasta la desobediencia civil que bildu tiene en sus estatutos porque también estamos en contra de la vulneración de derechos humanos y quien más está vulnerando los derechos humanos

a decenas de miles de personas que nos hace que tengamos que lamentar en nuestras ciudades y pueblos fotografías dantescas es así también realmente dantescas

con los cristales que no minimizamos porque es muy duro tener que asistir a desahucios que tienen que ver con políticas que manan de la troika porque es muy duro

y ahí también sería bueno que la sensibilidad que la enorme sensibilidad que esta cámara puede llegar a demostrar con algunos temas y nosotros nos sumamos a ella para que vuelva a quedar claro

podamos hablar de ellos pero a la vez podamos decir que más grave todavía si cabe es que una persona se suicide en sarriko hace un año y medio porque la desahucian de su piso y que

la misma valentía de llamarles minoría violenta si lo son o de llamarles personas que no respetan la democracia si no lo hacen y sin embargo en ese debate no nos encontramos esa

no nos encontramos esa empatía no nos encontramos ese exceso de celo y sería bueno que también ahí lo tuviéramos porque si lo vamos a tener con esto y se puede tener y probablemente se debe tener también habría que tenerlo con todo lo demás probablemente si no entendemos eso seguiremos haciendo ejercicios de condena o de rechazo que serán necesarios pero que no solucionaran nada porque como ha señalado quien me ha precedido en el turno de la palabra esto sistemáticamente se viene produciendo en muchos lugares

sobre cuáles son los mundos en los que vive eh bildu yo no sé cuáles son sus mundos mi mundo es bastante plural y seguramente lo que voy a decir ahora no sea algo que solo he escuchado yo probablemente lo haya escuchado mucha gente en esta cámara

lo estima pertinente a través de las redes sociales cuántas veces viendo las noticias en televisión o en prensa hemos oído alguien declamar cerca de donde estábamos nosotros no sabemos como esto no revienta

y el hartazgo por qué no intentamos analizar cuales son esas causas para intentar evitarlas y nosotros tenemos

nuestra posición es muy clara y muy alineada con la defensa de todos los derechos humanos para todas las personas y el mayor vulnerador de derechos humanos el mayor vulnerador de derechos humanos es quien con sus políticas sacrifica y lanza a la periferia de la sociedad a una parte de los ciudadanos para seguir acumulando beneficios de manera no solo deshonrosa sino absolutamente injusta esa es la fotografía real y esa es la fotografía de los grandes destrozos que al conjunto de la sociedad no solo vasca sino que diría europea le está provocando

nos vamos a limitar a reproducir el debate que hasta ahora estamos teniendo aquí y nos limitaremos a hablar de los daños materiales y lo vuelvo a decir otra vez para que quede claro no compartimos rechazamos esas prácticas esas actuaciones violentas no tenemos ningún problema en decir que esas actuaciones violentas

con el país que queremos construir pero eso en sí mismo no lo soluciona y supongo que en eso podríamos estar todos de acuerdo y podemos decir

pero insisto tengamos también esa fina sensibilidad esa epidermis tan sensible para que cada vez

con b de esta sociedad por las políticas que emanan de la troika seamos capaces de alzar tanto el verbo y de alzar tanto la voz y diremos que esos cien mil euros son muchos y lo son y también son muchos y también de esa ciudadanía

para que los señores de la troika reciban ese agasajo en el palacio guggenheim y no son datos que nos inventemos nosotros también lo señaló la consejera también ese es mucho dinero y también ese dinero lo pagamos todos los vascos y las vascas para algo que además parece

parece que el entusiasmo no era una lectura compartida

esa cita y también podremos seguir hablando de la actuación policial sobre si fue proporcionada o no

que señalaban si había sido más o menos relajada más o menos condescendiente

más o menos que la situación alcanzara esas dimensiones que alcanzó hay incluso declaraciones que decían y eran de una representante del partido socialista que la policía vasca tenía temor a que por una operación policial o una actuación policial pudieran desencadenarse o pudiera acabar en una situación como la de íñigo cabacas

que una actuación policial llevada a un extremo desde luego no deseado pueda acabar con una vida no es mucho más importante evitar que eso pase en cualquier circunstancia que otro tipo de cuestiones que están ustedes entremezclando en el debate

también hay que señalar y también lo señala eh bildu que todo ese dispositivo tan amplio y policial que se tuvo del que también nos dieron cuenta a través de los agentes es curioso que en esa lógica de los anillos para que de el señor de los anillos y parece que está claro donde estaba saruman que era en el guggenheim

a protegerles a ellos quizás tendrían que estar protegiéndonos a nosotros y a nosotras de sus políticas pero en cualquier caso una vez incidido y reincidido en este debate y en no sé cuántos más sobre los daños materiales

al menos en la medida que evitó que estemos hablando de lesiones graves fue una actitud proporcionada también se seguirá hablando de la caracterización de quienes

violenta hoy se ha utilizado más minoría violenta que en días posteriores como hizo el propio portavoz del gobierno cuando hablaba de minoría radical violenta y antisistema y es probable

pero además de ser radical y antisistema algo con lo que yo no tengo ningún problema en identificarme

y la caracterización se hace con una intencionalidad y también eso hay que señalarlo

termino mostrando la solidaridad de eh bildu con todos los damnificados por lo que ocurrió el tres de marzo y por lo que ocurre todos los días por las políticas de la troika

en sus comercios o en sus inmuebles y por todas las personas que sienten destrozadas sus vidas con las políticas inhumanas y crueles de la troika y mostrando también nuestra solidaridad con los heridos

con todas aquellas personas que tienen que sufrir las políticas

el señor iturrate si es posible que se celebre un evento de estas características sin que haya incidentes y seguramente es complicado impedir

es cierto que es complicado que podamos lograr

pero las preguntas pueden ser otras señor iturrate es aceptable que ante los actos vandálicos producidos se trasladara semejante

trasladara semejante imagen de inacción es irrelevante el hecho

contundentemente la actuación de su policía y de la nuestra y en concreto de sus mandos políticos

como asumibles las quejas de viandantes comerciantes ciudadanos no ya contra las acciones violentas algo que ha sido habitual en nuestra historia

siempre han elevado su voz contra las acciones violentas pero es aceptable que en este caso incluso hayan elevado su voz especialmente

podemos aceptar como asumibles por lo tanto estas críticas desde luego señor iturrate estos ciudadanos no sintieron próxima ni cercana

ni próxima ni cercana no sintieron ni próxima ni cercana

actuales de nuestra policía los abandonaron los dejaron abandonados son aceptables las declaraciones del gobierno vasco en las que afirmó que el objetivo se cumplió puesto que bilbao no ardió en llamas son aceptables estas declaraciones no podemos esperar algo más de eficacia por parte de nuestra policía es aceptable que la consejera no haya reconocido

no haya dicho que efectivamente hubo errores y que estos errores deben corregirse de cara al futuro el señor iturrate ha planteado que quizás hubo

bien pues quizá pueda votar a favor de nuestra transaccional que pedimos que

asuma estudie lo que ha ocurrido y tome medidas para que esto no vuelva a ocurrir lo cierto es que la consejera no hizo ningún tipo de autocrítica es irrelevante el hecho de que el único grupo que no ha criticado la actuación de la ertzaintza haya sido el grupo que no condena claramente los actos vandálicos

señor matute sino las agresiones y en todo caso usted ha criticado más a la troika que las acciones violentas esto también es un hecho de manera contundente las acciones violentas porque hubo una mayoría de ciudadanos allí representados en esas manifestaciones que

pacífica y democráticamente contra las políticas de la troika y eso es respetable pero es que hubo una minoría de acciones violentas que usted

a intentar dar la sensación de que todo era básicamente lo mismo y que incluso esos incidentes o esas acciones pudieran estar

mientras haya determinadas situaciones injustas es decir desahucios

laboral las desigualdades existentes mientras existan determinadas situaciones injustas determinadas prácticas violentas son al menos comprensibles y esto nos parece inaceptable porque vivimos en una democracia y además

acciones violentas son un hecho injusto son un hecho injusto que tiene que ser criticado contundentemente es decir viene usted a decir algo así como que mientras no vivamos en un mundo ideal

mientras existan determinadas situaciones injustas hay que entender y hay que comprender que haya ciudadanos dispuestos a romper escaparates y esto me parece que es

inaceptable para cambiar las situaciones injustas para acabar con los desahucios para acabar con la precariedad laboral tenemos la política tenemos

los parlamentos y tenemos la movilización ciudadana claro que sí movilización ciudadana pero pacífica y democrática ese es el cauce para mejorar la sociedad no

violentas sean auspiciadas impulsadas por minoritarios o por mayoritarios y esto no lo han dejado ustedes claro señor matute no lo ha dejado claro en fin para terminar porque sobre este asunto ya hemos hablado largo y tendido se cumplió al menos el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y por lo tanto es nuestra obligación recordar al departamento de seguridad que de cara al futuro corrija la actuación llevada a cabo en bilbao actúe de otro modo

evite la impunidad y para terminar claro que sí eficacia proporcionalidad y profesionalidad

me parece injusto que la consejera de seguridad en la interpelación que yo le realicé viniera a acusar a upyd de pretender

o una policía violenta o agresiva me parece claramente injusto no pretendemos eso lo dijo en la interpelación no queremos eso queremos una policía

no es para posicionarnos sobre las actuaciones de la troika porque eso como he dicho en mi primera intervención se debatió en esta cámara

patentes y no voy a decir cuál es la posición del partido socialista porque ya he dicho que muchos muchos socialistas vascos nos manifestamos en contra aquí y en las calles de bilbao de una manera pacífica si estamos aquí hablando de esto es porque se produjeron incidentes incompatibles desde nuestro punto de vista con

derecho a la manifestación porque es incompatible protestar contra los desmanes de la troika con hacerlo de manera violenta y por eso estamos aquí

en mi primera intervención para condenar los hechos que ocurrieron y para manifestar nuestra solidaridad con quienes sufrieron

proporción claro donde tenemos las discrepancias es en cómo se actuó el gobierno dice que actuó de la única manera posible de la mejor manera posible

nosotros no vamos a reclamar jamás actuaciones desproporcionadas de la policía para asegurar la seguridad

lo que ocurre es que desde nuestro punto de vista creemos que la actuación que hubo el día tres de marzo tiene mucho que mejorar y para mejorar no hay más punto de partida que la reflexión el análisis y la asunción

porque como he dicho también en mi primera intervención la constatación de los destrozos

tendría que hacer reflexionar sobre que algo falló en la planificación y la dirección del dispositivo del operativo de aquel día eso es lo que nosotros queremos incorporar elementos de debate elementos de crítica para mejorar y la enmienda que hemos

va a eso a que se admita de que puede mejorarse porque

a las preguntas que usted nos ha hecho yo le contestaría con otras es posible aprender de los errores y mejorar la seguridad de la ciudadanía es posible

única manera posible es posible aminorar los efectos hacia la población

eso es lo que nosotros queremos plantear que se deben y porque estamos convencidos de que se puede mejorar y porque estamos convencidos de que se podía haber actuado mejor por eso

y pongamos en marcha elementos de rectificación para que estas cosas no vuelvan a ocurrir

con el departamento del dispositivo son precisamente quienes jamás avalan

quienes como he dicho antes ni siquiera han condenado actuaciones contra la ertzaintza y esto a nosotros nos preocupa yo no sé a usted

pero en cualquier caso para nosotros es un punto de preocupación importante porque no vaya ser que ustedes coincidan con estos señores

es la que no actúa porque nosotros no estamos de acuerdo con eso estamos de acuerdo en que actúe con proporción estamos de acuerdo que actúe con eficacia pero que no actúe

la mejor policía es la que no actúa si actúa la policía se producen altercados no estamos de acuerdo con eso creemos que con proporción que con límites se puede perfectamente aminorar los efectos que contra la población
tienen este tipo de altercados y nada más eskerrik asko unzalu jauna

gracias señora presidenta bien muy brevemente

para dirigirme al señor matute ya

en nombre de su grupo en nombre de bildu usted aquí hahecho lo que hace siempre lanzado el discurso de siempre que le vale para todo le vale para todo ese discurso anticapitalista da lo mismo de lo que se hable

condenan pero eso sí luego en el ayuntamiento de bilbao no firman precisamente ese acuerdo que el resto de los grupos hicieron para condenar los actos vandálicos y como siempre hacen por supuesto ha hecho una

una equidistancia un todos hay que condenar todo lo que se produjo ese día todo es criticable y en alguna ocasión aquí no sé si se lo he llegado a oír pero en otras ocasiones bildu también ha dicho

puestos en libertad eso sí aunque se hayan dedicado

a amedrentar a los ciudadanos a poner su seguridad en riesgo

son una víctima de esa troika que usted hoy aquí

para todo con relación a la celebración del foro yo muy brevemente es verdad que en el partido nacionalista vasco uno no sabe si carne o pescado porque hay algunos que estaban encantados de que el foro viniese a bilbao y lo conozco de primera mano porque

en el ayuntamiento de bilbao aquí el señor lehendakari dijo

ni carne ni pescado pero en fin más allá de la celebración del foro

que hay dos responsabilidades señor iturrate claro que las hay la de los actos violentos que evidentemente la responsabilidad es de quienes lo cometieron

pero luego la otra responsabilidad es la de la organización del operativo y esa era responsabilidad del gobierno vasco y yo lo dije aquí el otro día se sabía y lo ha dicho usted también por

de otros foros porque los servicios de información así lo habían

era más que previsible que se iban a producir incidentes que más allá del ejercicio legítimo del derecho a manifestación aprovechando eso se iban a producir incidentes

que si es posible dar una seguridad absoluta complicado yo puedo estar de acuerdo

complicado pero es que para eso está el departamento de seguridad del gobierno vasco para organizarlo y para organizarlo bien y para evitar esos incidentes y si se producen pues para en el momento en que se empiecen a producir actuar

es que se produzcan los primeros incidentes a la altura de la gran vía de bilbao y los incidentes lleguen

sin que la ertzaintza haga nada hasta el sagrado corazón

y la señora consejera no nos convenció en esa comparecencia y usted tampoco y usted tampoco

si ustedes lo consideran un éxito pero claro solo lo consideran ustedes bueno ustedes y ya lo han dicho aquí también y estos señores que normalmente

siempre siempre y sin embargo en esta ocasión están

pero salvo ustedes y estos señores los ciudadanos los comerciantes los hosteleros de bilbao

los agentes algo sabrán también evidentemente ellos no lo tienen que organizar pero sabrán algo

todos todos dijeron que era posible haber actuado mejor todos menos usted y el departamento de seguridad que dicen que fue brillante que fue un éxito la actuación claro difícil mejorar cuando uno no hace autocrítica y ustedes han considerado que

mire yo se ha dicho también aquí pero quiero reiterarlo evidentemente

con eficacia tiene que actuar con profesionalidad tiene que actuar sometiéndose a los protocolos que están establecidos pero tiene porque es la única la única que en nuestro estado de derecho está autorizada para el ejercicio de la fuerza y cuando el ejercicio tiene que ser realizado para garantizar
la seguridad de los ciudadanos tiene que actuar y no mantenerse impasible nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea

señorías el grupo nacionalista mantiene su enmienda a la totalidad y no ha transaccionado con ustedes porque ustedes han

la situación y lo sucedido en bilbao con el único objetivo

ese es el objetivo de las proposiciones no de ley presentadas por mucho que ustedes hayan querido

de espíritu colaborado ustedes desde el minuto uno desde que presentó usted la proposición no de ley antes o inmediatamente después

sin esperar a que esta se produjese empezaron a zumbar al gobierno

de no sacarle y hoy también voy a tener la decencia de no sacarle cosa que usted debía tomar nota y yo repito

pueden garantizar la seguridad absoluta pueden ustedes lo han hecho ustedes cuando han tenido hombre al señor maneiro

le pueda hacer sombra en ese tema pues se puede esperar una actuación de ese tipo pero en ustedes tienen ustedes

respalde sus criticas de hoy por supuesto que se han producido errores la consejera lo reconoció

y que estamos en un proceso de mejora continua de evaluación continua para reforzar un modelo policial claro y especificado

pero lo vamos a hacer con proporcionalidad y responsabilidad como lo hemos hecho mire ustedes han querido

y han repetido una y otra vez todos han criticado todos se han opuesto mire todos no el fiscal superior del país vasco ayer ayer mismo

que le suponga al señor maneiro se ha referido a las criticas de la actuación de la ertzaintza en las protestas por el foro económico en bilbao y ha señalado que desconoce

pero ha defendido la proporcionalidad en la actuación policial y ha destacado que por lo menos no hubo heridos calparsoro criticó que se causasen daños en entidades públicas y comercios pero ha asegurado que prefiere eso a que los agentes de la ertzaintza hubieran cargado y hubieran generado allí una situación

las asociaciones de comerciantes de bilbao señorías bilbao dendak

y el ayuntamiento de bilbao una nota conjunta que dice que el operativo policial fue responsable y proporcional y el balance de la jornada fue satisfactoria ya que las estrategias policiales y de contención evitaron que se produjera ningún

a los propios incidentes y a los cuerpos policiales por lo tanto todos no todos no comparten sus criticas ni tan siquiera aquellos a los que ustedes han puesto como testigos señora llanos en esta tribuna para decir que las compartían pero qué dice usted

del partido popular que está gobernando en españa y me habla usted de carne o pescado pero después de ciento cuarenta y cinco pelotas de gomas disparadas en ceuta

en las aguas del estrecho después de los incidentes del veintidós de marzo en madrid con un centenar de

con días semanas de incidentes en el barrio gamonal en burgos en llamas con decenas de pescadores apaleados hace quince días en la coruña pero de qué estamos hablando qué están pidiendo a este gobierno qué responsabilidades están pidiendo cuando en seattle en mil novecientos noventa y nueve cuatrocientos cincuenta detenidos y millónes de dólares de pérdidas en la cumbre del ge veinte en génova en el dos mil uno decenas de heridos un muerto

en londres dos mil nueve decenas de heridos un muerto y cientos de miles de euros de pérdidas

enmienda dice claramente que es posible mejorar e insta mejorar dentro del plan

señor unzalu a usted le preocupa nuestra coincidencia con eh bildu en este tema

de mi enmienda con eh bildu ni estoy detrás de cuál es su posición en todo caso en este tema es escandaloso su cinismo político y el de su grupo escandaloso o sea es ha llegado a decir que parece que ustedes comparten con eh bildu que la mejor policía es esa que no existe si usted sabe que está mintiendo

es cinismo político es tan escandaloso como si yo en esta tribuna le dijese a usted que no lo voy hacer que

o lucha contra el fraude después de haber repetido hasta la saciedad

que son quienes han mantenido y han apoyado el mayor de los fraudes fiscales en este país el impuesto revolucionario es que sería igual si yo salgo a esta tribuna y le digo lo mismo usted ha actuado aquí desde el cinismo político

no nosotros condenamos lo sucedido en bilbao nos solidarizamos con las personas que sufrieron daños en bilbao e instamos
al departamento a que continúe en la labor de mejora continua y aprenda de los daños amaitzen joan

para que las personas que pretendan provocar incidentes sepan cómo actuar
en eso no vamos a caer señor unzalu gracias eskerrik asko iturrate jauna

yo comprendo que el señor iturrate se enoje cuando ve que le interpretan de manera errónea en lo que se ha expresado pero eso pasa en estos debates y con todo hoy se lo ha hecho el señor unzalu a usted a nosotros nos lo han hecho todos pero vamos la posición que yo

de rechazo de cualquier tipo de actuación violenta incluida la de los destrozos en la gran vía la venimos manifestando desde el cinco de marzo lo que no ha sido obstáculo para que hace cuatro días el secretario del euskadi buru batzar dijera que mientras otros destrozaban bueno que el lehendakari estaba dentro del guggenheim y mientras otros destrozaban el centro de esa ciudad

fíjese fíjese cómo nos sentimos cuando siendo tan claros como somos el secretario del euskadi buru batzar dice que el modelo bildu es ese bueno en cualquier caso

y sino también señalaba el representante de upyd que nos ha faltado más contundencia o que podíamos haber sido más claros y explícitos para que no pareciera que esto es todo es lo mismo si es que todo no es lo mismo señor maneiro si es que nosotros

haga que haya quien entienda que siempre hacemos el discurso anticapitalista y de la troika porque para nosotros la mayor fuente generadora de violencia

creemos que tiene sentido más si cabe cuando los actos que se produjeron en bilbao los actos de violencia que se produjeron en bilbao en la gran vía

la mayoría de la ciudadanía sufre en sus propias carnes esa es la realidad

yo no dudo de que muchos socialistas se manifestaran por las calles de bilbao

para hacer toda la foto para hacer la foto completa y no se trata de que aquí eh bildu o aquí yo como portavoz en este momento tenga que hacer no sé qué lectura

yo siempre he manifestado una posición bastante clara con el tema de la violencia

en la lectura de la democracia y de la policía cuando pudieron caerse de algún caballo en algún tiempo remoto

solamente decir en cualquier caso que nosotros no hemos condenado

porque décimos una y otra vez que lo de la condena en todo caso le tocaría a los jueces y queremos decir al hilo de esto

con quien sufre daños ya sean humanos o materiales sería lanzarnos a una caza de brujas

que se estén produciendo detenciones donde creemos sinceramente que se están buscando a veces chivos expiatorios para saciar

que algunas de las detenciones nada pueden tener que ver salvo

en el mismo tiempo con los incidentes pero se les está presentado probablemente para aplacar esa crítica

que nuestro discurso viene a ser algo así como que mientras existan determinadas situaciones injustas

me habría hecho ocupar un mayor centralidad en sus intervenciones y tener más

como hoy aquí pero hasta que no se revierta la exclusión y la desigualdad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible erradicar la violencia se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos oprimidos pero sin igualdad de oportunidades

que tarde o temprano provocará su explosión cuando la sociedad

a una parte de sí misma no habrá programas políticos ni recursos policiales

que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad esto no sucede solamente porque la inequidad o la desigualdad provoca la reacción violenta de los excluidos del sistema

y económico es injusto en su raíz probablemente habría sido más contundente empezar así habría sido más contundente pero no más lejano a los sentimientos y a la identidad religiosa de muchos de ustedes porque esto lo dijo hace tres meses

a la sazón el papa francisco primero besterik ez eskerrik asko